egutegia egiteari ya sabemos lo importante que es para el pnv la elaboración de programas el cumplimiento de calendarios y la concreción en los compromisos por lo menos cuando se trata de exigirlo a los demás hay abundantísima literatura al respecto especialmente de la mano del señor joseba egibar azote de herejes que ha afeado

diputado general de gipuzkoa sus carencias respecto a programas plazos o compromisos

concretamente al lehendakari patxi lópez le decía que el único lehendakari sin programa de gobierno

y que las comparecencias de sus consejeros fueron y lo leo literalmente

sin concreción alguna y esto lo podríamos suscribir tal cual respecto al gobierno actual

no se gobierna no se lidera se está en el poder y si me permite el copyleft hoy creo que a día de hoy podríamos decir perfectamente lo mismo

ha pasado el tiempo y el tiempo que pasa no se recupera máxime cuando no se toman decisiones desde el liderazgo de una institución que se deben tomar

aktibitaterik izan edo bere hitzekin esateko su actividad legislativa fue casi nula

en este momento sus propuestas para el programa legislativo estas propuestas que además mencioné en la presentación del programa de gobierno hoy hace una semana

estas propuestas van a contemplar en primer lugar la respuesta a los compromisos

adoptados en el programa de gobierno y además van a incorporar también las propuestas propias de cada departamento en respuesta a las demandas y necesidades sociales que deben atender

de forma previa al próximo día quince de junio y a partir de esta fecha estas propuestas departamentales serán debatidas en el seno del consejo de gobierno y una vez

será remitido a este parlamento mi compromiso es por lo tanto señorías poder comparecer en sede parlamentaria una vez que el programa legislativo haya sido aprobado por el gobierno y quiero adelantar que este compromiso va a ser realista en la medida en que yo hacía referencia también

del programa legislativo de manera realista tomando la referencia de lo que habían sido legislaturas anteriores y vamos a plantear por lo tanto un programa legislativo que podamos cumplir durante la legislatura considero señorías por último que puede resultar

con motivo de un planteamiento de calendario legislativo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

hortik hasiko naiz como digo

vasca es la única comunidad del estado que junto con ceuta y melilla no tiene una ley de la vivienda

su creación con carácter universal donde se garantice el derecho a la vivienda de todas las personas un derecho que por otra parte es constitucional pensamos que esta ley tiene que ser un instrumento para evitar la especulación

especulación que ha sido uno de los elementos o que ciertamente no el único que ha incidido en

a normativizar y a limitar el mercado de la vivienda que siempre es insaciable para que un elemento tan básico como es la vivienda

y no sea un objeto de trueque con afanes especulativos

aurrekontua larria da esta nueva ley la nueva ley de vivienda podría contemplar por ejemplo la creación de un organismo público de vivienda o la reconversión

para establecer un alquiler social unificando los

y por supuesto eliminando los desahucios para lo cual contemplamos que las entidades financieras pasen la titularidad o pasen la gestión

a una entidad pública que pueda permitir que se haga un sistema

de alquiler gestionando el uso y

este calendario se refiere a un proyecto de ley que también menciona el gobierno vasco que es la ley municipal

lege de bases de régimen local madrilen onartua eta

y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades son elementos del municipio los siguientes el territorio la población y la organización

eta hemen ondo dakigunez eta guztiok esaten dugu hori pertsonentzat egiten dugu politika y precisamente porque ese es el objetivo que se dice

será tan importante dar marcha atrás en la ley de

ayudas sociales en la ley que afecta

fundamental desde nuestro punto de vista por qué porque en el año dos mil once

con la ayuda del partido popular se hicieron severos recortes en la ley del año dos mil ocho sobre las ayudas sociales se hicieron dos cambios importantísimos

se amplió de uno a tres años el plazo de registro en el censo para poder acceder a la renta y segundo se redujo en un siete por ciento la cantidad a percibir y estos recortes que se hicieron para cuadrar presupuestos

y además influyó también este recorte en la prestación complementaria de vivienda donde se estableció un tope y se puso un tope de doscientos cincuenta euros y estos recortes los ha mantenido o por lo menos no hay nada que nos indique lo contrario

gobierno nacionalista pensamos que hay que retroceder que hay que dar marcha atrás en estas medidas que suponen un obstáculo enorme

más personas afectadas por la crisis económica

de hacer política para las personas eso es lo que se nos dice y eso es lo que queremos creer y eso es lo que en concreto la señora

para proteger y mejorar el bienestar social de las personas pues empecemos por cambiar por modificar esta ley

consejeros señor lehendakari comparece usted supuestamente para explicar el calendario legislativo comparece porque así se lo ha exigido un grupo parlamentario sino

no lo habría hecho usted señor lehendakari no ha elaborado

legislativo y obviamente tampoco tenía intención de presentarlo más allá de leer durante su comparecencia de la semana pasada las leyes que usted prevé a esta cámara no sabemos exactamente cuándo de hecho ya digo que es lo que usted hizo la semana pasada leer aquellas leyes que supuestamente usted traerá a esta cámara aunque ya digo que sin plazos específicos

concreto la razón para no haber elaborado un calendario legislativo es obvia usted no se ha querido comprometer en nada para que no le puedan es decir para que no le podamos echar en cara el incumplimiento de los plazos de ese supuesto calendario legislativo que sigue sin llegar que no existe a día de hoy

no podamos realizar nuestra labor de control señor lehendakari

el que usted no se haya comprometido el que usted no haya elaborado un calendario legislativo con plazos específicos evidencia

cobardía y a nuestro entender es un desprecio al parlamento que cinco meses después no lo haya hecho no puede usted señalarnos ya es decir cinco meses después de asumir el cargo de lehendakari qué es lo prioritario para euskadi

y lo menos importante no puede usted señalarnos ya cinco meses después sus previsiones no puede señalarnos ya cinco meses después plazos concretos no lo ha hablamos ya con sus consejeros

otra vez le tengo que volver a decir lo que ya le dije la semana pasada usted nos presenta un listado de leyes que usted piensa traer a esta cámara no sabemos exactamente

para sacar ni una sola de estas leyes y este es el asunto que usted a día de hoy cinco meses después sigue sin tener apoyos

y negarse a dialogar y pactar con el resto de partidos políticos que usted nada puede hacer estando solo qué quiere hacer y con quién

nuestra opinión la cuestión mentalícese señor lehendakari

exactamente qué quiere hacer y con quién puede hacerlo está en su derecho

soledad pero en ese caso si esta soledad se mantiene en el tiempo podemos ir dando la legislatura por finalizada por tanto su problema sigue siendo el que ya le explicamos durante la comparecencia de la semana pasada qué apoyos tiene para aprobar estas leyes y con qué apoyos cuenta para tomar las medidas que euskadi necesita con qué apoyos cuenta señor lehendakari aquí en este parlamento más allá de que le apoye para diferentes cuestiones

el asunto es con qué apoyos cuenta en esta cámara qué pretende hacer y con quién va a hacerlo cuáles de estas leyes podrá usted aprobar

y con qué contenido quiénes cree usted que van a acompañarlo

qué seguimos a la espera por lo tanto cinco meses caracterizados por la más absoluta soledad prepotencia falta de diálogo

ensimismamiento y ombliguismo al parecer todos los críticos somos boicoteadores mientras tanto insisto ni un solo apoyo retirada del proyecto de presupuestos pacto de estabilidad que se pospone y ahora cumbre en ajuria enea que ni siquiera busca un pacto estable al parecer sino sacar adelante

una serie de medidas concretas que bien podrían haberse traído a esta cámara pero que no se han traído no necesitamos fotos señor lehendakari sino

esto es lo que euskadi necesita haga todas las reuniones que usted quiera pero no olvide que es en este parlamento donde necesita apoyos

euskadi seguirá esperando la crisis se seguirá agravando el desempleo seguirá creciendo y los ciudadanos seguirán sufriendo un lehendakari

se nos ha vuelto a atacar estos días pasados por algunos de sus compañeros de partido de mantener una actitud boicoteadora es ciertamente curioso el presidente el partido nacionalista vasco afirma que nunca llegaron a plantearse

y a la vez nos acusan de mantener una actitud boicoteadora es ciertamente curioso usted nos excluye inicialmente de un posible pacto de estabilidad

una actitud boicoteadora por lo tanto señor lehendakari ustedes están en minoría

esos acuerdos y el contenido de esos acuerdos pero al menos usted ya podrá decir

para hacer una cosa o la contraria sin embargo a día de hoy estando solos y efectivamente usted plantea una serie de leyes que puede traer

atenderemos al contenido de estas leyes para posicionarnos sobre

terminan llegando a esta cámara nosotros queremos decirle que más allá de que podamos compartir

es indispensable traer a esta cámara queremos compartir con usted y con ustedes la necesidad

nuestra opinión euskadi necesita traer y debatir

determinadas leyes cuanto antes a esta cámara le cito algunas

pensamos que es indispensable que se apruebe cuanto antes una ley de vivienda y yo quería preguntarle por este asunto si va a traer una ley de vivienda y con qué contenido

y cuándo lo haría si piensa traer a esta cámara la aprobación de una ley de transparencia que creo que a día de hoy sigue siendo indispensable

si usted se plantea traer a esta cámara o no y con qué contenido

indispensable abordar la modificación de la ley de territorios históricos queremos instarle por lo tanto

traiga a esta cámara la modificación de la ley de territorios históricos con el objetivo de acabar con las duplicidades y las ineficiencias y clarificar competencias

y las diputaciones forales nos parece absolutamente fundamental también traer cuanto antes una ley municipal treinta años después

una ley municipal en euskadi por lo tanto a nosotros esta ley nos parece absolutamente fundamental una ley municipal que sitúe a los ayuntamientos

a los ayuntamientos autonomía financiera una ley municipal que sirviera para clarificar de una vez las competencias que los ayuntamientos deben

que permita participar a los ayuntamientos en el consejo vasco de finanzas y una ley municipal que

también recoja la posibilidad de fusionar aquellos municipios más pequeños que siguen existiendo en euskadi

sigue siendo fundamental y una modificación también de la ley electoral para conseguir que el voto de los ciudadanos vascos valga exactamente igual

donde resida también le pedimos nosotros que traiga a esta cámara la modificación de la ley electoral por lo tanto yo me he querido centrar en esta comparecencia en estas cinco leyes que consideramos absolutamente fundamentales

ley de transparencia ley electoral para modificarla ley municipal y modificación de la ley de territorios históricos nos parecen

otra serie de decisiones que se siguen posponiendo en el tiempo como es la necesidad de redimensionar racionalizar el sector público

para reducir drásticamente todas esas empresas públicas entes fundaciones que siguen existiendo

los meses pasan y esto sigue sin hacerse y nos parece absolutamente fundamental también que en esta legislatura la fiscalidad se debata y se acuerde en este parlamento para lo cual habría que introducir todas las modificaciones legales que sean necesarias

absolutamente indispensable pero en todo caso señor lehendakari estamos en lo previo si no tiene usted apoyos lo que presente

nos acusan de boicotear no sé qué como si ahora estuviéramos defendiendo algo distinto de lo que siempre hemos defendido como si no hubiéramos demostrado siempre ser perfectamente

que hasta ahora arrimar el hombro dar lo mejor de nosotros mismos proponer propuestas e ideas plantear iniciativas las leyes que sean necesarias estar dispuestos al diálogo y al acuerdo porque es nuestra obligación y siempre lo hemos hecho así eso sí señor lehendakari nuestro lema es el siguiente ni boicots ni cheques en blanco arrimar el hombro sí

ni cheques en blanco seremos críticos pero constructivos

gracias señora presidenta muy buenos días lehendakari señorías

desde su comparecencia en relación con el programa de gobierno que usted preside

y en la que tuvimos ocasión de manifestarle nuestra posición la posición del partido popular del país vasco en el que le exigimos liderazgo y a la vez

de un necesario plan de estabilidad hoy usted nos ha expuesto su calendario legislativo dieciseis proyectos de ley que su gobierno pretende remitir

contenido de su comparecencia permítame que haga referencia a una cuestión de forma

prácticamente igual al que hoy estamos utilizando después

suyas señor lehendakari permítame la expresión sin pena ni gloria utilizaba el último turno para plantear su propuesta estrella el meollo del que usted venía a contar en esa comparecencia una vez que ya los grupos parlamentarios no podíamos replicarle y darle nuestra opinión es decir se aprovechó legítimamente es cierto pero se aprovechó

este reglamento en una clara estrategia de comunicación que hizo prevalecer por encima de la voluntad de sumar apoyos mediante el debate en esta cámara

sino también de debilidad como quiera que la situación de minoría continúa la pregunta de hoy como hace una semana es cómo piensa sacar adelante estos proyectos con qué apoyos contará

yo le pido que no espere a la última intervención para hacer el planteamiento

el que cuenta que lo haga en la réplica porque además de ahorrarnos tiempos y la lista de reproches nos permitirá ir al grano y quizás pueda servir para sacar algo productivo de este debate dicho esto

aprobar en consejo de gobierno y quiero decirle señor lehendakari que si los presupuestos son la expresión numérica de la acción de un programa de gobierno los proyectos de ley son ese instrumento necesario para hacer para plasmar la acción de gobierno y tengo que recordar la función principal de esta cámara una vez escuchada la relación de proyectos tengo que decirle

que podría trasladar los argumentos que utilizamos en la intervención del grupo popular de la semana pasada ya que no dejará de ser una mera declaración de intenciones

en esta cámara para sacarlos adelante y correrá la misma suerte que el primer proyecto que ustedes han remitido a este parlamento que son los presupuestos de la comunidad autónoma vasca

la que aprobaron para garantizar la paga extra de los funcionarios por lectura única

que realmente el principal proyecto de un gobierno

y ese sabemos la suerte que ha corrido serán rechazados o bien ocurrirá otra cosa que tampoco es buena para un gobierno y es que después del trámite parlamentario después de todo el debate saldrá totalmente distinto y en la dirección distinta

se matice el proyecto y otro que se le de la vuelta como a un calcetín a ese proyecto que remite el parlamento esta es la cuestión principal a la que usted tiene que hacer frente y explicar

cómo se plantea dar cumplimiento al calendario legislativo que se han marcado me gustaría que usted lo contestará a poder ser señor lehendakari en su siguiente turno por otro lado quisiera hacer algunas precisiones en primer lugar esta relación de proyectos de ley no son ninguna novedad

los clásicos como por el hecho de que los consejeros allá por el mes de febrero en sus comparecencias ya nos expresaron

su calendario legislativo yo tuve además ocasión de asistir a la comparecencia del señor erkoreka

cuál era el calendario legislativo de su consejería y por lo que he visto el resto de consejeros inicieron lo mismo porque supongo que no sería una ocurrencia de los consejeros

dentro del gobierno de cuál iba a ser el programa junto con las acciones de cada una de las consejerías por tanto lo que no comprendemos es esta especie

los proyectos que van a poner encima de la mesa cuando ya nos lo contaron en febrero y además usted nos habla de un procedimiento nuevo que es el de la memoria esto de la memoria

es que son los informes que deben acompañar a un proyecto de ley cuando llega aquí

a quién afecta qué se quiere conseguir con ese proyecto de ley cuál va a ser su afección económica etcétera por tanto lo que le quiero decir con esto es que ya estamos en tiempo de descuento que ustedes ya deberían de estar trabajando en esos proyectos

no para sacarse la foto no para salir diciendo ese vamos a sino que deberían ya estar haciendo y ya estar trabajando

que además y por lo que ustedes nos han venido diciendo en los últimos meses como lo tenían todo tan claro

muy elaborados y vendrán cuanto antes en segundo lugar algo que ya se ha dicho aquí pero que creo que cuando estamos hablando de un calendario es lo que importa cuándo los van a traer porque claro ese calendario legislativo dos mil doce dos mil dieciséis ya podemos descartar el dos mil doce nos quedan tres años cuatro años por delante y tendremos que saber cuándo van a venir

y otra de las cosas cuáles van a ser las prioridades porque es verdad que dentro de esa relación de proyectos de ley tenemos

importantes proyectos de ley para vertebrar este país

darle una continuidad para que en un momento de crisis en el que estamos ahora se puedan aprovechar para situarnos mejor para poder salir de la misma y por tanto también nos gustaría saber cuál va a ser esa prioridad y por otro lado también tengo que decirle señor lehendakari que me ha parecido

el listado de proyectos y lo tengo que decir porque el número de proyectos es conservador dieciséis si he entendido que es para toda la legislatura

es realista es conservadora es prudente también yo creo que llevada por la situación de minoría en la que están sobre todo si tenemos en cuenta y lo comparamos con el número de proyectos de ley del calendario legislativo del gobierno anterior que eran como cuarenta y que luego se corre el riesgo de

de frustración en frustración porque no se consiguen traer y en esto le tengo que decir

virtud y de esa necesidad de apoyos en esta cámara

pocos proyectos pero esperemos que eso sí con las propuestas del grupo popular en este caso pues se puedan aumentar porque creo que hay un amplio margen para poder traer leyes que son necesarias para esta comunidad y que seguramente se debatirán

yo señor lehendakari poco más tengo que decirle porque

y lo que tenemos que saber para si realmente nos podemos creer o no este calendario legislativo y las intenciones de este gobierno es saber cómo piensa usted aprobarlos en este parlamento yo creo que esa es la cuestión yo creo que podemos volver a enredarnos y podemos otra vez traer todos los argumentos que trajimos el jueves pasado pero creo que no serviría de mucho más porque yo insisto lo que queremos es escucharle a usted a poder ser en la próxima intervención para que podamos debatir con usted

y saber realmente cuáles son sus intenciones y termino mi intervención como la empezaba diciéndole que desde el partido popular le exigimos

señor lehendakari liderazgo y también a la vez lo que le décimos es que tiene la mano tendida del partido popular para aprobar propuestas reales en un momento complicado y que sirvan para salir de esta crisis y para que los ciudadanos de verdad perciban

está a su servicio y no para otras cosas muchísimas gracias eskerrik asko quiroga andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

gracias presidenta bueno el grupo socialistas vascos

como defendió la pasada legislatura la virtud de presentar un calendario legislativo de verdad porque pensamos que es un instrumento que expone con claridad las intenciones de un gobierno que indica su voluntad de legislar en qué materias con qué ritmos con qué calendarios y además acompaña la tarea de los grupos parlamentarios

flexible y de colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo y por supuesto también como un instrumento evaluable sometido por supuesto al control de la cámara y quiero recordarle que fuimos los socialistas los que recuperamos este hábito que se había perdido en las décadas de gobiernos de coalición nacionalista

así que nos parece bien y le felicitamos porque el lehendakari actual siga este camino de ofrecer una propuesta legislativa al parlamento

pero pensamos que es manifiestamente mejorable en la forma y en el fondo hace una semana el lehendakari ya anunció en esta tribuna y avanzó sus intenciones nos habló de dieciséis leyes

solamente quiero recordarle que el anterior gobierno remitió a esta cámara cuarenta leyes señora quiroga remitió cuarenta leyes no llegó a cuarenta como usted dice no remitió cuarenta leyes registradas en esta cámara y nos explicó

que se parece mucho al empleado por su predecesor pero nos dijo también que daba un plazo hasta el quince de junio para exponer su propuesta definitiva entiendo que en un consejo extraordinario puesto que el quince de junio es sábado

tremendamente especial a ese calendario pero desde luego no vamos a ser nosotros los que nos volvamos exigentes con los plazos no seremos nosotros los que vayamos hacer el pnv en esta cámara para eso ya están otros no vamos a volvernos más papistas que el papa

pues sinceramente preferimos dejárselo a otros a aquellos que no presentaban calendario legislativo pero se lo exigían a los demás a aquellos que pusieron por escrito

que un gobierno debe remitir a la cámara su programa de gobierno con sus proyectos de ley y planes en el plazo de dos meses desde la investidura fíjese usted

estamos en mayo parece que aquello que se pedía a los demás no se cumple cuando a uno le toca ejercerlo

del pnv hace tres años el que por cierto no tuvo en la década anterior y el que el gobierno del pnv tampoco tiene ahora porque en dos meses como ustedes nos exigían a nosotros no ha estado en este parlamento el programa de gobierno porque el programa de gobierno que usted expuso en esta cámara

no incluye los proyectos de toda la legislatura y porque no están los planes esperemos que estén

y le vamos a conceder evidentemente el beneficio de la duda vamos a esperar a que se apruebe este calendario que lo haga con memorias individualizadas

con indicación de los sectores sociales afectados con estimación financiera con previsión de plazos y por supuesto con prioridades y con ritmos

y vamos a confiar en que lo complete con una propuesta de planes y de actuaciones significativas igualmente documentadas e igualmente esperamos que ese calendario actualizado cada semestre en función de las necesidades que vayan surgiendo de los mandatos parlamentarios o de la necesaria adecuación de plazos que se puedan ir produciendo

relativas sobre todo a sus propias contradicciones entre lo que exigían y lo que hacen hay algunas lagunas que estamos viendo en el adelanto que ha realizado usted se ha referido a dieciséis proyectos nuevos y otros dos que surgen de iniciativas

creo que se ha olvidado no sé si con intención o sin ella de otra ley en tramitación también a iniciativa socialista que ustedes se comprometieron en este parlamento a completar con otra ley me refiero a las referidas a la regeneración de la vida política en concreto a nuestra propuesta de regular las incompatibilidades de altos cargos y a la ley de transparencia que el señor erkoreka nos dijo que tenían previsto plantear y digo que no sé si es intencionada porque precisamente a raíz de aquella iniciativa

ya se sabe para mejorar lo que hicieron los socialistas que por supuesto nunca podrán ser tan eficaces como el pnv eso ocurrió en febrero estamos en mayo y aún no sabemos nada hoy ni nuevo código ético ni suscripción del anterior olvido de la ley que ya está en tramitación y amnesia sobre la comprometida de la ley de transparencia

el grupo socialista lo va a traer a esta cámara porque creemos que debemos mejorar sustancialmente en el ámbito de la transparencia especialmente en los momentos políticos que vivimos y de la clarificación de la condición del político

de la propuesta legislativa sin entrar en debates políticos recurrentes en las últimas fechas pero es bueno recordar que las leyes se aprueban en este parlamento y que por lo tanto deben responder a una coherencia de actuación en la política del gobierno

que el gobierno presenta en la cámara y después como le han repetido todos los que me han precedido en la tribuna

que definir cuál es su proyecto y después intentar cuajar los consensos necesarios para sacarlas adelante dicho de otra forma las leyes

que todavía están pendientes de trabajarse los socialistas le vamos a sugerir algo que no eche por la borda el trabajo adelantado en la pasada legislatura

porque hay textos avanzados que llegaron a remitirse a la cámara otros que estaban pendientes de elaboración por los técnicos de los distintos departamentos

por mucho que fuera impulsada por nosotros creo que son aprovechables no hagan como con la ley municipal el proyecto que anuncia podría ir más rápido si aprovechan el texto que ustedes bloquearon

ya hemos comprometido un plazo suficiente para que el gobierno entregue en sede parlamentaria el proyecto de ley pero lo sustancial

la redistribución competencial con mayores capacidades para los ayuntamientos la dotación económica para desarrollarla que es la clave de la revisión del entramado institucional que es de verdad

desde hace tres décadas también le planteamos que incluyan otros proyectos

el gobierno que le precedió trajo a esta cámara una ley de vivienda se ha planteado ya también

en contar aquí las virtudes y la necesidad de una ley de vivienda en un momento como el actual en que el problema de la vivienda se ha convertido en un problema social acuciante y casi uno de los primeros en la preocupación ciudadana

en el momento en el que vivimos para qué para reforzar el papel social de la vivienda

a esas miles de personas que se están ahogando en sus hipotecas y que necesitan también solución y un techo para cobijarse y en ese sentido sabe que hemos presentado una iniciativa

en este sentido que dé una cobertura más completa a este asunto cuya solicitud de resolución como usted sabe es cada vez más un clamor social no hace

a las demandas de los afectados que no da respuesta al problema

a que esto se solucione han recuperado ustedes la idea sobre la ley de puertos o la del estatuto de la mujer agricultora

en el trabajo ya realizado en la pasada legislatura pero echamos en falta algún que otro proyecto sectorial no hay una ley de cambio climático

el dictamen sobre la ley en la tramitación parlamentaria con las aportaciones por cierto de todos los grupos y a falta simplemente de ratificación o la del paisaje una propuesta pionera en el ámbito parlamentario o la de función pública que fije las condiciones en las que debe desarrollarse esta o una ley de juventud que no prosperó legislatura bien le planteamos que recuperen estos textos y que aprovechen el trabajo hecho para agilizar también la presentación de estas leyes en el parlamento en definitiva les venimos a pedir que no tengan complejos en reconocer que se hicieron muchas cosas en la pasada legislatura por parte del partido socialista y en tomar como referencia ese trabajo

no tengan complejo tampoco en reconocer que fue el gobierno anterior el que recuperó un compromiso

un calendario legislativo y de planes estratégicos también un calendario flexible es verdad adaptado a las circunstancias es verdad que se corre el riesgo de incumplirlo por supuesto

en fijación de las verdaderas prioridades del gobierno y sobre todo en transmitir a la sociedad y a esta cámara cuáles son las intenciones reales de verdad

del desarrollo retórico que se tenga con ellas las intenciones reales de un gobierno para

para mostrar también una voluntad de compromiso inequívoco con este parlamento de rendición de cuentas y de fijación de prioridades porque una vez presentado el calendario le a queda usted la parte complicada

la de ser capaz de coser complicidades la de ser capaz

su visión de país su modelo de país sus prioridades políticas y una vez hecho esto intentar que las leyes salgan con el mayor acuerdo posible
y ahí le estaremos esperando señor urkullu eskerrik asko pastor jauna

ninguna preocupación en cuanto a lo que pueda ser mi intervención de cierre utilizando la misma estrategia que

y también los portavoces de los grupos parlamentarios sabrán para qué utilizaron la comparecencia en la presentación del programa y si ante esa utilización de la comparecencia del lehendakari para la presentación del programa el lehendakari utilizó también su intervención de cierre

se refería solamente al programa de gobierno pero en todo caso no se preocupe usted por lo que hoy pueda ser el desarrollo de mis intervenciones en el tratamiento del calendario legislativo insisto que quiero dejar clara constancia de que se trata de objetivos e iniciativas a adoptar por el gobierno a lo largo de la presente legislatura que tiene una incidencia o un compromiso de carácter legislativo

va a ser realista he dado a conocer el procedimiento que estamos siguiendo para la elaboración del programa legislativo y no es una innovación por parte de este gobierno pero creo que hemos de ser también realistas en lo que supone la tramitación

he dado a conocer las iniciativas contempladas en nuestro programa de gobierno y que en algunos casos o en algunos de los casos pueden llevar aparejado un compromiso de planteamiento de proyecto de ley

que nos marcamos una relación de proyectos legislativos por lo tanto adecuado ajustado a la realidad y que vamos a ser capaces de cumplir y digo que vamos a ser capaces

ha hecho como ejercicio la pasada legislatura efectivamente llegó a haber

treinta y siete proyectos legislativos que no prosperaron pero de cincuenta y nueve que habían anunciado que iban a ser los proyectos legislativos y en algunos casos

ni siquiera se iniciaron y no es suficiente con decir que efectivamente

proyectos pendientes como si aquí fuera donde estuviera la carencia y quedaron treinta y siete proyectos pendientes de los cuales diecinueve de los treinta y siete que quedaron pendientes no entraron con la debida documentación señor pastor

ni crear falsas expectativas y creo que desde el realismo nuestra intención es sencilla es simplemente cumplir con nuestro programa por eso nuestros objetivos de proyectos legislativos serán proporcionados y conformes con nuestra

el gobierno por lo tanto remitirá su programa legislativo a este parlamento dando con ello respuesta a los objetivos e iniciativas que planteamos la semana pasada y quiero proceder

de carencias o ausencias que sus señorías

en representación de los grupos parlamentarios que la oposición ha indicado también cuáles podrían ser proyectos de ley que

interesados en que se tramitaran yo comienzo por lo que es el programa que nosotros como gobierno hemos presentado y comienzo por el ámbito propio de la administración pública uno de los compromisos de este gobierno es avanzar en una administración eficaz y transparente

que lleve a cabo una gestión moderna y responsable de los recursos públicos y es ahí donde yo sitúo también el planteamiento de un proyecto de ley de transparencia han transcurrido treinta años desde que se sentaran las bases iniciales de la administración pública que constituyeron la ley de gobierno y la definición del sector público

de la hacienda los cambios sociales legislativos organizativos y tecnológicos que hemos experimentado desde entonces como sociedad y también como administración han sido enormes por ello consideramos que es necesaria una futura ley de administración pública vasca

incluyendo conceptos tan necesarios y actuales como la administración electrónica la atención ciudadana la transparencia la participación

la eficacia en la administración no se puede limitar a este gobierno sino que también tiene que ser extensiva otras administraciones públicas vascas

que complemente debidamente los servicios públicos en beneficio de nuestra sociedad en este contexto es urgente para el gobierno que superemos

el gobierno traerá los proyectos de ley que este parlamento

el parlamento apruebe definitivamente por ejemplo un proyecto de ley municipal

desde una perspectiva consensuada con los agentes que intervienen en su configuración me voy a referir a continuación al ámbito económico

precisa de acuerdos estables con otras instituciones que conduzcan a escenarios de mayor certidumbre y que se soporten en unas bases regulatorias sólidas de las relaciones económico financieras esto son por lo tanto los objetivos esenciales que se plantean en el ámbito de la hacienda

con la comisión mixta del concierto económico o con el propio concierto económico el objetivo que plantea el gobierno es lograr una suficiencia recaudatoria que permita contar son servicios sociales de calidad y al mismo tiempo vivir configurando una fiscalidad propia

en este mismo ámbito es necesario abordar la clarificación del ordenamiento jurídico de euskadi en materias propias de la hacienda general del país vasco

que posibiliten los desarrollos reglamentarios de las cajas de ahorro y entidades de previsión social voluntaria la actualización de la normativa en materia de control económico y contabilidad

en el ámbito más específico del crecimiento sostenible la política medioambiental tendrá un lugar destacado partiendo del amplio desarrollo

en este gobierno adecuado plantear como iniciativa modificar la ley actual de suelos contaminados con el fin de trasladar la experiencia obtenida desde la entrada en vigor de la vigente ley al diagnóstico actual y al previsible futuro de este vector ambiental en euskadi las infraestructuras también tienen su seria incidencia tanto en aspectos medio ambientales como en económico y de sostenibilidad del país la mejora de los puertos vascos y sobre todo de su gestión

por lo que planteamos la ley de puertos vascos así como también planes específicos en dicha materia por otra parte

y este es un sector que aporta mucho valor cualitativo a nuestra sostenibilidad ambiental a nuestra vertebración territorial al necesario equilibrio entre la población rural

el sector agrario necesita también avanzar en modernización en innovación

adaptación a las nuevas realidades y retos como la incorporación de la mujer o la garantía del relevo generacional con este objetivo es

como la ley del estatuto del joven agricultor y agricultora en el ámbito más relacionado con el desarrollo humano comenzamos por la educación el gobierno se compromete

la excelencia educativa ello requiere de partida y ante todo

aplaudiendo lo qué es el pacto educativo existente en la comunidad

actualizando un acuerdo estable que dé coherencia y estabilidad al sistema educativo vasco este es el objetivo que nos planteamos y lo desarrollaremos también a través de iniciativas como la ley de formación profesional o la ley de aprendizaje a lo largo de la vida que también pertenece

de este gobierno en el ámbito sanitario la cultura de la prevención y el fomento de la salud se señalan como dos de nuestros objetivos prioritarios en el programa de gobierno

creemos pertinente la revisión de la ley sobre prevención asistencia

el gobierno plantea actualizar la visión de esta realidad contemplando lo que ha venido a denominarse nuevas adiciones san prudencio ya pasó no

entre las que podemos citar los problemas vinculados a dependencias con herramientas tecnológicas o problemas de ludopatía siguiendo con el desarrollo humano

el objetivo del gobierno es promover un sistema deportivo más equilibrado y de calidad elaborando un proyecto de ley de regulaciones de las profesiones del ámbito del deporte y como última

más moderna y al servicio de nuestra sociedad y esta es la razón de ser de nuestra iniciativa en orden a la modificación del derecho civil foral vasco en el ámbito del derecho sucesorio y en el régimen matrimonial voy a finalizar haciendo referencia al ámbito de la paz los derechos humanos y la convivencia reitero que vivimos una oportunidad única en nuestro país una oportunidad que debemos ser capaces de aprovechar contribuyendo a una paz justa y con memoria y también por lo tanto nuestro programa contiene por ello

en legislatura anterior como es el proyecto de ley del instituto de la memoria y convivencia basado en un primer acuerdo insisto sobre políticas públicas de memoria y tomando como base la proposición que fue consensuada en la anterior legislatura señorías habiendo hecho la explicación de lo que es el compromiso en el programa de gobierno que no es cerrado sino que también estamos dispuestos a escuchar como estamos tomando referencia de lo que son las iniciativas que los grupos parlamentarios de la oposición estiman pertinentes siendo que algunas de ellas ya están insertadas en lo que son

planteamientos en el programa legislativo y siendo también que no estamos nosotros como gobierno para echar por la borda trabajos anteriores seremos receptivos desde luego

se haya hecho en esta misma cámara para poder aprovechar con suficiencia lo que haya sido esa realidad y adecuarla a la realidad presente eskerrik asko

a la ciudadanía atalean baina behin ere ez da aipatzen ley de consulta edo ley de participación ciudadana solo se habla de desarrollar y difundir herramientas participativas y de elaborar un libro blanco de la democracia y de la participación ciudadana

y de participación ciudadana que ya existen a nivel internacional eta gero aipatu egiten da una implantación electrónica de participación

del programa electoral del pnv y del programa de gobierno

es el nuevo estatus político para euskadi y que se contempla que tiene que tomar parte

aunque también es cierto que este punto aparece y desaparece porque desapareció del programa de gobierno y volvió a aparecer en la participación oral del lehendakari

estudiarse en profundidad cómo se va a articular esta participación ciudadana cómo se va a llevar adelante este proceso cómo se va a consultar cuál va a ser la fórmula para recabar la opinión de la ciudadanía en un tema que es tan trascendental

y que unas ventanas electrónicas también se quedan cortas para articular este proceso

cómo valora esta fórmula si va a valorarla por medio de un plebiscito que por cierto

que puede estar en manos de la propia ciudadanía no necesariamente de las instituciones que recaba un sí o un no y que no está legislado en el estado español o si la fórmula va a ser un referéndum que sí está legislado en el estado español pero que por supuesto es consultivo pero no es vinculante o cuál va a ser la manera en que se va a dirimir que se va a dilucidar quién decide al final

dónde reside la soberanía quién tiene la potestad para poder decidir en última instancia quién es

y eso enmarca con el marco que se me mencionaba anteriormente hauxe da hain zuzen ere interesatzen zaigun eremua zein den

de contenidos yo quiero insistir en lo que he planteado en el primer turno sin voluntad de diálogo y sin voluntad

usted señor lehendakari usted y su gobierno no podrán sacar adelante ninguna de estas leyes y esto es lo que a día de hoy más nos preocupa si va a mantener la actitud que han mantenido hasta ahora de falta de diálogo y falta de acuerdo

o si por fin va a asumir que efectivamente ustedes se encuentran en clara minoría y por lo tanto tienen que llegar a comprender que ustedes son un partido como los demás

necesitan dialogar y acordar con el resto

a día de hoy cinco meses después del cambio de gobierno esta es la pregunta que ustedes tienen que realizarse y responder si por fin cinco meses después

y acordar con el resto de partidos políticos de la oposición

no sé si llevarán a cabo una estrategia de boicot en nuestro caso desde luego que no nosotros seremos críticos pero constructivos como lo he dicho antes

y tirar para adelante o algo así pero el asunto es que no puede hacerlo solo este es el asunto y por lo tanto insisto debe dialogar

y es indispensable dialogar y acordar con el resto de partidos políticos cosa que hasta ahora no se ha hecho y nosotros esperamos que este gobierno y este

cambien de actitud ya digo cinco meses y medio después del cambio de gobierno nosotros nos mostramos dispuestos a dialogar

siendo críticos pero constructivos en base siempre a proyectos y a contenidos concretos y dando prioridad a lo realmente importante a lo que realmente necesita euskadi y a lo que realmente necesitan los ciudadanos vascos a día de hoy descartando

consultas soberanistas aventuras soberanistas o nuevos estatus que únicamente nos llevarían a la soledad

esto hay que descartarlo definitivamente y es lo que nosotros

centrarse en lo importante este gobierno y este lehendakari deben centrarse en lo importante

en salir de la crisis y crear empleo estable y digno impulsar medidas de regeneración democrática y de transparencia debe modernizar internamente euskadi con la modificación de todas las leyes que sean necesarias

internamente este gobierno debe centrarse en atender a los ciudadanos con menos garantizar el estado del bienestar y poder garantizar también el acceso a una vivienda digna creo que esto es lo fundamental que este gobierno o cualquier gobierno en una situación como la actual debería hacer a esto se debería dedicar

nosotros hemos señalado algunas leyes que consideramos

otras pero yo le he hablado de la ley de vivienda de la ley de territorios históricos de la ley electoral de la ley municipal o de una ley

lo más importante a día de hoy creo que a esto deberían dedicar todos sus esfuerzos e insisto nosotros estamos dispuestos a dialogar

estos que yo le he señalado sacar a euskadi de la situación de crisis económica en la que se encuentra rescatar a los ciudadanos garantizar el estado del bienestar

y mejor sistema institucional para euskadi esto es lo que creo que es importante a día de hoy para euskadi y para cada uno de los ciudadanos vascos

segunda intervención y que nos haya desgranado con más yo creo que

la fórmula por la que va a trasladar a este parlamento los proyectos de ley y también

nos ha sonado bien esa prioridad en la que habla usted de economía y de avanzar en el estado de bienestar

ese avanzar en esa consulta y en ese nuevo estatus porque como ya le dije hace una semana

no le encontrará en cualquier caso yo después de las intervenciones que he oído aquí no vamos a entrar en una guerra de cifras que eso es lógico es decir que aquellos que han estado en el gobierno pues quieren poner de manifiesto lo bien y lo mucho que hicieron

en este parlamento sabemos lo que aquí se aprobó sabemos lo que aquí se debatió

hubo un gran impulso en la actividad legislativa porque precisamente el gobierno de patxi lópez contó con

que fue el partido popular la que dio esa estabilidad parlamentaria aunque en los últimos tiempos lo único que recibimos por parte del partido socialista

pero es verdad que eso fue así y yo creo que también en ese desarrollo y en esa

muchos de los retrasos fueron ocasionados porque algunos procedimientos legislativos son lentos yo creo que la cojua tuvo una actividad

algunas reformas de esos procedimientos legislativos y mejorarlos porque creo que hay cosas que no es tanto por que el gobierno no quiera sino porque

más lentos y lo ralentiza pero en cualquier caso creo que esto es de justicia reconocerlo es decir que la actividad legislativa del gobierno anterior fue una actividad yo creo que importante pero también no solo por el número de proyectos que se trajeron y se terminaron

nos debemos fijar en el número sino también en el peso es decir en el contenido de esos proyectos ahí yo creo que

a proyectos que están pendientes pero bueno veremos que es lo que ocurre en esta legislatura también le han puesto encima de la mesa señor lehendakari

y que podrían ser aprovechados tal y como le han dicho aquí para que en esta legislatura vinieran más rápido y quizás tuvieran un consenso mayor y más rápido para salir adelante ahora yo también le quiero avisar de una cosa es decir que

el ofrecimiento que es el partido socialista de euskadi tal y como están en este momento de bandazo para aquí bandazo para allá

como algo que debía hacerlo y que no podía ser de otra manera que es la modificación de la constitución y luego cuando desarrollaron el partido popular por ley esa modificación constitucional el mismo partido socialista le dijo que no que votaba en contra lo que era necesario

y no apoyaron cuando estaban en la oposición con lo cual yo esto se lo digo por si acaso

yo creo que es la clave en esta legislatura yo creo que todos estamos hablando de lo mismo es la estabilidad y realmente esa estabilidad lo que necesita son acuerdos y mire señor egibar yo coincido con usted y además recojo el guante de esa reflexión que hacia usted en cuanto a la estabilidad

la responsabilidad en la consecución de esa estabilidad que por supuestísimo que es lo que necesita ahora mismo euskadi para salir adelante claro que si pero mire es que las urnas como usted bien dijo

y han colocado esa responsabilidad en el partido nacionalista vasco

y es verdad que a todos nos exige una responsabilidad

a todos nos están mirando los ciudadanos para ver qué es lo que estamos haciendo

en este momento a quien está midiendo la sociedad es al señor urkullu es a él

si realmente esa confianza mayoritaria que depositaron en el partido nacionalista vasco

a la altura de las circunstancias y oiga en los últimos meses la verdad es que yo creo que

la sensación que tienen que tener es de cierta frustración eso es así porque efectivamente los acuerdos los tiene que liderar el señor urkullu y la situación es que a día de hoy

porque ayer la reunión de los diputados generales con el lehendakari

la estabilidad y sobre todo sacar algo en concreto porque yo creo que ayer lo que se puso encima de la mesa son acciones concretas ahora vamos a ver cómo se materializan y sobre todo la lealtad con la que actúan aquellos que ayer se comprometieron porque parece que algunos también tienen vértigo y que cuando llegan a un acuerdo en una mesa luego cuando salen fuera

yo creo que este momento requiere de responsabilidad y de poner en valor algo que siempre ha sido

después es consecuente con lo que ha dicho y lo mantiene porque aquí

los focos el que tiene la responsabilidad pero también es cierto que todos los demás tenemos que hacer ese esfuerzo

que estamos a la altura de las circunstancias que es verdad que es un momento

sufren mayor desgaste tanto por acción como por omisión esta es la historia es decir que no tenga usted miedo señor lehendakari porque es que aquí el desgaste es tanto para el que hace y propone

que asuma ese riesgo yo le veo demasiado temeroso yo le veo

y en este momento señor lehendakari es el momento en el que hay que demostrar si uno realmente está comprometido con euskadi si está comprometido con sacar adelante euskadi pese a lo que se pueda dejar por el camino de su imagen y

de esa valoración que yo creo que está pesando mucho más en usted a la hora de actuar durante estos meses la valoración de los ciudadanos que sacar adelante

es la estabilidad yo coincido en que es un elemento importantísimo en esta situación

es que usted pretenda trasladar y lo vienen haciendo desde el principio de la legislatura toda la responsabilidad para la consecución de esa estabilidad

si es que a ustedes les han votado los ciudadanos que les han votado y les han dado los escaños que les han dado para que ustedes gobiernen este país pues gobiernen por favor gobierne el pnv y el señor

tome decisiones gobierne y esfuércese usted en conseguir la estabilidad porque la estabilidad no es un bien en sí mismo

no hacer nada esperar a ver lo que ocurre y sobre todo para lograr estabilidad se necesitan acuerdos políticos y para lograr acuerdos políticos cuando uno gobierna tiene que optar tiene que decidir tiene que priorizar tiene que eliminar unas opciones y optar por otras no vale venir aquí y decir me vale todo lo que me dice usted lo que me dice usted y lo que me dice usted si me da los votos necesarios

eso es sobrevivir y un gobierno no está para sobrevivir está para sacar el país

y por lo tanto uno tiene visiones de país y en este parlamento hay unas cuantas todas legítimas por supuesto pero distintas también y ustedes tendrán la suya yo quiero saber cuál es la suya y con quién quieren compartirla para logra la estabilidad

un modelo soberanista a ultranza que es una visión legitima del país que tiene bildu y justo al contrario por ejemplo hay quien tiene un modelo fiscal y quien tiene otro

compañeros de viaje y tendrán que apostar sobre todo por determinadas políticas de país las que entiendan

búsquense el socio si les parece perfecto el partido popular pues perfecto si les parece bildu bildu y sino con nosotros o con todos los grupos parlamentarios pero algo tendrán que decidir no vale esperar a que les venga por sí solo y sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa mucho

para que en esta situación de emergencia nacional y de crisis económica profunda todos seamos responsables y echemos el resto pero ya se lo dije al señor lehendakari hace unas fechas en este parlamento es que la crisis económica en euskadi no comenzó el mismo día que el señor urkullu fue investido a lehendakari a este país en el dos mil ocho

la crisis económica en euskadi a pesar de que ustedes lo negaron y durante toda la legislatura anterior hubo crisis económica vaya que si la hubo

dónde estuvo ahí la responsabilidad del pnv en poner palos en las ruedas en deslegitimar al gobierno en descalificarlo permanentemente

en obstruir cuantas iniciativas institucionales se ponían encima de la mesa porque llama poderosamente la atención

hoy y la que tuvieron antes de ayer por lo tanto esta bien nosotros asumimos la parte de responsabilidad que nos toca como oposición

porque el mundo no ha crecido ni ha existido ni ha salido aquí porque ustedes hayan llegado al gobierno el país tenía problemas en el dos mil ocho y en el dos mil nueve y en el dos mil diez y en el dos mil once

y ustedes parece que no se enteraban o lo usaban simplemente como efecto de alarma social y ahora todos tenemos que ser corresponsables de una situación

en primera persona bien yo creo que eso es importante que quede claro y entramos después en otras materias que comentaba

usted decía nosotros vamos a ser realistas como si nos quisiera decir es que ustedes no lo fueron no es así

más de veinte con determinada importancia

le reconozco su oferta de diálogo y de recoger propuesta de los demás pero en fin no se puede decir este es mi calendario legislativo pero si no les gusta tengo otro que es lo que ha venido a decir en su primera intervención no se preocupe usted que esto tampoco es lo definitivo después podrá haber otra cosa

y después hablamos de las que nos interesan a los demás pero por favor con cierta claridad

de una vez definan qué país quieren qué proyecto quieren llevar adelante y desde luego no trasladen a los demás más responsabilidad de la que tenemos que nos toca una parte y la asumimos pero convendrán conmigo en que la mayor responsabilidad la mayor cuota la tiene quien gobierna y como usted dice las urnas

la mayoría minoritaria que les da en esta cámara y con esa tienen que gestionar

de cómo pretenden ustedes sacar a este país de la crisis económica y cómo pretenden a la vez proteger a los desfavorecidos y de dónde

el estado de bienestar y dónde piensan ustedes que se tiene que debatir por ejemplo esa política de ingresos si aquí como se aprobó en este parlamento para fijar la normativa general o se niegan ustedes a aceptar ese planteamiento ustedes tienen que retratarse todavía en muchos temas

señor pastor yo creo que somos digo somos rehenes de nuestras estrategias del pasado y que

en su intervención esta última no nos lleva es que dice usted es que ustedes tuvieron una estrategia de obstrucción al gobierno anterior

con independencia de que tuvieran el pacto con el partido popular

todas ellas por lo menos razonadas diciendo en el capítulo de gastos dónde quitábamos para proponer

se nos aprobó salvo una técnica y el partido nacionalista vasco se abstuvo fíjese si podíamos tener posición política

discurso incluso teniendo garantizada la aprobación con el partido popular para que el partido nacionalista vasco dijera no

abstuvimos nos abstuvimos y es verdad que también había una relación con el entonces

es verdad pero nosotros cuando estamos hablando de estabilidad y estamos hablando de corresponsabilidad también estamos hablando

yo creo y repito que somos rehenes de esa situación porque yo cuando le escucho también al señor maneiro

no es voluntaria yo le puedo hasta entender porque usted

espero que no se aísle desde luego nosotros voluntariamente no nos vamos a aislar buscamos entendimientos

pero también es verdad que ha transcurrido un tiempo que la sociedad nos observa a todos y que el pacto psoe pp y pp psoe

de ellos o de las dos formaciones políticas y también de upyd y basta ver la última encuesta del cis

se está jugando en otros ámbitos la general pero la operación política aquella a tocado a su fin y no ha pasado tanto tiempo

y esa operación política ya en este país no va a ser alternativa yo puedo entender

por un tiempo porque también es verdad que emerge otra formación política que creía que iba a ganar al partido nacionalista vasco

o que podía condicionar hasta tal punto la política del partido nacionalista vasco que en esa combinación de lucha institucional y lucha de masas estamos como estamos

del programa y del calendario legislativo como dos piezas de un mismo conjunto

y también para quien desarrolla por primera vez por ejemplo una labor de oposición en esta cámara o gobierna en otras instituciones en el sentido siguiente esa teoría dice que si tú no adoptas las decisiones

la inercia te a va tragar y eso le puede pasar al gobierno y le puede pasar a la oposición también

el gobierno ha presentado el programa y el compromiso de un calendario legislativo y se va a traer a esta cámara akordioak aurkitu beharko ditugu

decía que hay nueve líneas

porque sintonizamos con las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía la ciudadanía nos observa evidentemente y nos calificará

porque aquí cada cual tiene su responsabilidad y es intransferible la responsabilidad de quien gobierna y la de quien practica la oposición

en las periferias de cada formación política a ver cómo han visto el hecho de que toda la oposición por unas razones y las contrarias no hayan permitido o se le haya obligado al gobierno vasco a retirar su primer proyecto de presupuestos algunos han tenido que dar más de una explicación y van a tener que seguir dándolas

porque la sintonía la soledad y la comunicación en todo caso hay que hacerla con

y este gobierno sí está conectado con la sociedad eskerrik asko egibar jauna amaitzeko lehendakari jaunak dauka hitza

señor maneiro yo me quedo con su última intervención porque en la primera intervención

sus proyectos de ley que desearía ha tenido usted una primera y una tercera parte en su primera intervención que realmente era lo mismo que la semana pasada

de la intervención de la señora quiroga también desgraciadamente para mí en este caso nuevamente reiterando lo de la soledad nuevamente

la semana pasada en cuanto a lo que es la asunción del desgaste en todo caso señor

con su última intervención en la que entiendo yo a mí no me gusta venir aquí a la tribuna a decir cualquier cosa e intento no decir cualquier cosa

usted es consciente de que aquí puede decir una cosa pero que realmente no es verdad

usted sabe perfectamente señor maneiro como el resto de portavoces parlamentarios cuál ha sido el ejercicio

para qué cuestiones hemos hablado con los portavoces parlamentarios cuál ha sido el esfuerzo de las consejeras y de los consejeros de este gobierno y sabe además que ni siquiera llevamos cinco meses por mucho que ustedes hayan insistido hoy

ni siquiera llevamos cinco meses y cuál ha sido el ejercicio de diálogo que ha tenido este gobierno con los grupos de la oposición insisto que me quedo con lo que es

en los contenidos del programa legislativo en los contenidos de los compromisos

a esta cámara en este sentido también apunto a la señora quiroga esta es la voluntad del gobierno y mire usted me reprochaba también la soledad en cuanto a la necesidad de estabilidad la responsabilidad del lehendakari simplemente quiero recordarle unas palabras de su presidente de partido del parlamentario señor basagoiti

cuando yo presenté el documento de bases complementario a lo que fue la negociación del proyecto de presupuesto lo que su propio presidente del partido popular

era difícil que nadie tuviera la no voluntad de atender lo que era el documento de bases y que era difícil que nadie

un proyecto de presupuestos en orden a lo que es un acuerdo de estabilidad y eso es lo que planteo también como planteé en el pleno de la semana pasada de lo que pueda ser la reunión de partidos políticos donde se hable de todas las cuestiones que pueden afectar e incidir en las cuestiones urgentes que apremien a esta sociedad

señor pastor yo creo que usted tiene que ser consciente también de las contradicciones en las que usted mismo incurre cuando interviene

y en un mismo punto del orden del día como es el punto que estamos tratando

la contradicción supuesta del gobierno vasco del lehendakari

del programa legislativo en su cumplimiento en un calendario determinado como si aquí ahora tuviéramos un plan b que no es lo que he dicho señor pastor no tenemos una alternativa a lo que es el programa legislativo que hemos planteado simplemente he dicho

están trabajando también en otras iniciativas más allá de las dieciséis que hemos reflejado en esta voluntad de programa legislativo pero no me puede usted decir

tenemos que ser concretos cuando usted mismo en su primera intervención ha dicho que un calendario legislativo tiene que ser flexible que tiene que ser revisable cada seis meses usted lo ha dicho

lo contrario de lo que ha dicho usted en la primera intervención gaurko agerraldi honetan gardentasun osoz gobernuaren proiektuen berri eman nahi izan egin dut

el resto de mi última intervención a subrayar cinco ideas la primera idea es compromiso y esta es la base de acción de este gobierno hemos recogido nuestros compromisos

vamos a cumplir los objetivos e iniciativas planteados en ese programa y que tienen una incidencia legislativa según el programa legislativo que he presentado también en el día de hoy

la segunda idea es la iniciativa todos los departamentos del gobierno están elaborando sus propias propuestas

que deriva de la anterior es el cumplimiento de lo comprometido pero a partir de esta base insisto señorías

y puedo adelantar por lo tanto que el contenido en nuestro programa legislativo será no modificado sino más amplio

la tercera idea es el realismo la pasada legislatura un total de treinta y siete proyectos como he dicho en mi segunda intervención no prosperaron en esta cámara

y recuerdo también que así como se emplaza este gobierno que no llevan ni cinco meses a traer un calendario legislativo en el plazo de dos meses el gobierno anterior

de las elecciones que fueron el uno de marzo al diecisiete de noviembre del año dos mil nueve cuando se presentó el calendario legislativo en todo caso los proyectos de ley que no prosperaron en la cámara en la legislatura pasada las razones son diversas pero la conclusión es evidente este gobierno va a actuar con realismo y no lo digo

hablo de que va a actuar con realismo es que vamos a plantear un programa que podamos cumplir que vamos a poner el foco en la viabilidad de las propuestas que remitamos a esta cámara la cuarta idea es el rigor un programa legislativo como el que vamos a proponer es más que un calendario con nombres de leyes y de fechas nos encontramos elaborando en el seno del consejo de gobierno un programa documentado

vamos a analizar con el máximo rigor ese programa de forma previa a remitirlo a esta cámara y el empeño va a ser que sea un programa viable y con este mismo rigor que solicito comprometo que el programa legislativo del gobierno os enviará por lo tanto a este parlamento el próximo mes de junio después del trabajo realizado por cada uno de los departamentos y la aprobación en el consejo de gobierno

la quinta idea también que me interesa destacar en el día de hoy es la actitud de escucha y de receptividad por parte de este gobierno hoy el gobierno ha escuchado a los grupos parlamentarios vamos a mantener esta actitud de escucha con la sociedad con las necesidades y con las demandas sociales y con los planteamientos de este parlamento por lo tanto

con los planteamientos que nos vengan de los grupos de la oposición como fueron

planteé al lehendakari en aquella legislatura y recuerdo las aportaciones que el

en cuanto a los diez ejes de actuación futura a lo largo de la legislatura el desarrollo de esos diez ejes de actuación

y por lo tanto la consecuencia también de ello en la relación con el presidente del gobierno español y sabe el partido socialista de euskadi y sabe el ex lehendakari que

en ningún caso puenteó al lehendakari ni secretario general del partido socialista de euskadi lo saben ustedes perfectamente lo sabe usted señor lópez perfectamente

presentó públicamente en cuanto a medidas urgentes la activación económica y para la activación también de la generación de empleo juvenil y el éxito que esas medidas tuvieron en cuanto al eco que recibieron por parte del gobierno en todo caso

de los planteamientos de este parlamento y de los planteamientos de los grupos parlamentarios nuestro planteamiento va a ser abierto y flexible a las aportaciones